arratsalde on con dinero público no se debiera favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda la única política de vivienda posible debiera ser el alquiler esta frase está pronunciada recientemente por el consejero de empleo

y como veremos este planteamiento que el gobierno viene haciendo desde el primer momento

y en otros momentos como cuando se plantea y se presenta el plan director de vivienda

efectivamente a la importancia a la preeminencia que tiene que tener la política de alquiler sobre la política de compra y no podemos estar más de acuerdo si bien es verdad que se somatiza planteando que esa transición

lo cual también podemos compartir sin embargo como digo estas manifestaciones chocan con la trayectoria con la trayectoria

porque para ello veremos que en el presupuesto de dos mil catorce

correspondiente se plantea el objetivo de vivienda de protección pública en alquiler para el dos mil catorce seiscientos viviendas no se ha iniciado ninguna y viviendas de protección pública en venta se plantea

viviendas iniciadas es decir este concepto tiene más brío que el del alquiler

se plantea un objetivo de vivienda de protección pública en alquiler de ochocientos y para la venta de novecientos cincuenta es decir estos planteamientos presupuestarios ya demuestran que no son concordantes con las manifestaciones que hace el gobierno

ciento veintiuno viviendas cuando se contemplaba que entre dos mil trece y dos mil catorce que tenían que haber iniciado mil trescientos y teníamos

ciento veintiuno también entre dos mil ocho y dos mil trece hemos sabido que han renunciado

que en un setenta y siete por ciento alego falta de financiación bancaria que este es otro problema también del que convendría hablar incluso hay una promoción en vitoria gasteiz

por falta de compradores por tanto la mayor demanda de alquiler sobre la compra la propia afirmación del consejero sobre la preeminencia del alquiler sobre la compra en vivienda de protección pública choca

promoviendo con la intensidad que se afirma en el discurso del gobierno en estos momentos las viviendas de protección sin comprador equivalen al dos coma seis por ciento del total de parte público en propiedad que

van perdiendo su calificación porque estaban sometidas a un plazo

variando el observatorio vasco de la vivienda dice que es una prioridad dar salida a los pisos desaprovechados

otras fórmulas los socialistas no es la primera vez

que las viviendas construidas para su venta que lleven más de doce meses sin adjudicar pasen al parque público de alquiler esta es básicamente propuesta que hace el grupo socialista pero no lo dice solo el grupo socialista lo decía el propio gobierno en su comunicación que acompaña al plan director cuando afirma en relación al fomento del alquiler que se propone acciones como el destino de exceso de viviendas en régimen de compra a régimen de alquiler o similares es decir

de planteamientos ahora se trata de articular esa convergencia de opiniones por tanto entendemos que es preciso materializar coincidencia de opiniones dando respuesta a la política de vivienda en alquiler por ahí

y de la que esperamos desde luego su apoyo hoy por hoy estamos muy lejos

que se planteaba como objetivo el gobierno y por lo tanto entendemos que a esto hay que darle un nuevo brío

una de partido nacionalista y otra de euskal herria bildu claro la enmienda que plantea el grupo nacionalista no permite en los términos que planteamos nosotros la propuesta ser asumida porque efectivamente entra en un desarrollo literal

nosotros queremos la concreción que hemos expresado en nuestra propuesta y respecto de la enmienda de modificación que plantea euskal herria bildu

no estamos en desacuerdo con ella no estamos en desacuerdo con ella que en realidad ya ha habido dos acuerdos anteriores en este parlamento que plantean porque ustedes lo que nos vienen a decir el segundo punto de su proposición

parece plantear que ese régimen de rentas del treinta por ciento de la renta del ocupante incluidas tasas y gastos de comunidad que no solo sea para estas viviendas que llevan más de doce meses sin adjudicar sino para todo el parque de vivienda claro no podía ser de otra manera

y no para los otros lo que le queremos decir a euskal herria bildu es que el problema esta en que el gobierno a día de hoy sigue sin cumplir los acuerdos parlamentarios

y del veintiséis de febrero del dos mil catorce por qué pues porque el siete de abril se adoptaba un acuerdo en el que

a fin de que el precio por metro cuadrado de viviendas de alquiler se adecue realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado

incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad adaptar la orden de tres de noviembre y sus respectivos reglamentos

etcétera etcétera es decir el planteamiento que recoge la enmienda de modificación lo hemos acordado ya incluso ustedes y nosotros en alguna transacción que no llego a prosperar

sino que se trata de una cuestión que ya la hemos aprobado y lo que le instamos al gobierno es a que cumpla aquellos acuerdos parlamentarios y eventualmente a este si resulta aprobado es decir en los términos en los que se

lo que haya que pagarse no solo en las viviendas que han de salir o debieran de salir del régimen de compra porque llevan

y además estamos viendo que esa es una tendencia creciente una tendencia creciente y por lo tanto la mejor manera la mejor manera de hacer verdad de hacer realidad

reviértase al parque de alquiler aquellas viviendas que a la vista de la renuncia existentes de que hay un parque

es verdad que lo que afecta aquí en este caso sería doscientos setenta y cinco de visesa porque

no tenemos los datos exactos no los ha facilitado el gobierno aduciendo que no hace seguimiento de ello y por lo tanto insisto en el hecho

de demostrar coherencia entre lo que se dice que se dice priorizaremos el alquiler es ante este estado de cosas revertir

público de vivienda que se plantea en compra que no ha sido adjudicado precisamente por renuncias una y otra vez para que pase

no es que no aceptemos lo entendemos de suyo pero hemos querido mantener en su integridad el texto que traíamos aquí precisamente

desfigurarlo o para que no diera lugar a una redacción de urgencia que desconfigurara el planteamiento pero en el contenido no es que estemos de acuerdo es que lo hemos

de acuerdo en alguna transacción que en su momento no prosperó por estas razones básicamente es por lo que entendemos que para dar respuesta

que hay una nómina cada vez mayor de solicitantes de vivienda en alquiler menor en lo que respecta a la compra porque estos son los dicterios del propio gobierno al que le pedimos también coherencia con lo que viene afirmando bueno

pásese al mercado de alquiler en el que sí hay verdadera demanda

de acudir al argumento una vez más economicista de que efectivamente eso puede suponer un quebranto en las previsiones presupuestarias pero es que hoy en día esas viviendas

ni tienen arrendatario que pague una renta y por lo tanto no están produciendo siquiera

por todas estas razones es por lo que pedimos apoyo a la propuesta que hoy traemos aquí nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

por delante en primer lugar la opinión de nuestro grupo favorable a la filosofía contenida o que subyace en esta iniciativa

producirse en el futuro es la ligada al programa de fomento de un parque público de viviendas en alquiler hacia lo que pudiéramos llamar el alquiler social de vivienda pero esta filosofía señorías no ha sido la seguida durante los últimos años por los responsables de la materia entre los que se encuentran tanto el grupo político

como de algunos otros que hoy la van a apoyar ambos tienen enormes responsabilidades en relación con lo que acontece hoy en día en euskadi en el sector de la vivienda

en régimen de venta allí donde no se necesitan y por el contrario no se hayan construido en las zonas donde existe necesidad de ese tipo de vivienda

crearon entidades del sector público con personalidad jurídica privada y dentro de estas últimas

con participación mayoritaria de la administración pública vasca entre ellas visesa visesa es una sociedad mercantil que depende del gobierno en cuyo capital participan como todo el mundo sabe kutxabank y caja laboral euskadiko kutxa

y en su actividad se rige por el derecho privado al igual que cualquier empresa privada ustedes crearon una herramienta para que actúe con arreglo a las normas de derecho privado

que se dedica a construir viviendas para posteriormente venderlas y ahora a continuación

y actuaciones propias de una administración pública estas empresas funcionan igual que los promotores privados

estos entes que forman el sector público estas empresas públicas tienen que cuadrar sus presupuestos acudiendo al crédito privado pero no obstante como todo el mundo sabe los prestamos hay que devolverlos en este caso los que visesa ha suscrito como promotor de viviendas protegidas destinadas a la venta por eso el cambio de régimen de compra a régimen de alquiler

sin analizar el impacto que eso supone en las cuentas de explotación de visesa hay que articular un escenario de tránsito que nosotros proponemos sea de dieciocho meses el cambio de calificación de vivienda protegida en venta y bien protegida en alquiler son medidas que tienen un costo

de las que casualmente quinientos se hallan en gasteiz concentradas en pocas actuaciones fundamentalmente en una de trescientos catorce viviendas para cuya financiación

a visesa no ya como promotora de esta concreta actuación sino que afecta a la propia existencia de la sociedad

por todo eso nosotros proponemos que en el primer punto de nuestra enmienda que se arbitren fórmulas para dar salida a las seiscientos viviendas que no se han vendido

a aquellas fórmulas que conlleven la recuperación de los recursos públicos empleados en la promoción y construcción de las mismas como son el alquiler con opción de compra la compraventa con

durante dos mil trece visesa ha puesto en marcha estas modalidades de adjudicación de vivienda mediante las cuales va dando salida

porque sería iluso pensar señorías que tal como se deriva de la propuesta del grupo socialista los ingresos derivados de los alquileres sociales son suficientes para financiar la incorporación de estas viviendas del parque de viviendas al de alokabide

la renta media real del alquiler social en álava es de doscientos veinte euros

nosotros entendemos que se necesita un cambio de paradigma en esta materia se necesita un cambio del modelo de política de vivienda y para eso estamos trabajando en la proposición de ley en ponencia técnica como todos ustedes saben se

que no se resuelve mediante el cambio de calificación de vivienda protegida en venta a

medida que no es sino un remedo una especie de imitación de la política de vivienda del régimen español y europeo heredero directo del franquismo como todos ustedes saben el reto consiste

entre los cuales por cierto más del cuarenta por ciento demanda una vivienda en propiedad en álava que es donde se concentra el mayor parte del stock de viviendas sin vender hay inscritos en etxebide

ese es el problema a resolver y este no se resuelve mediante la recalificación que se nos propone respecto a la determinación de los precios de alquiler de estas viviendas proponemos que se realicen de conformidad con la normativa regulada de los contratos de arrendamientos de las viviendas de protección oficial que se concreta en la orden de tres de noviembre de dos mil diez dictada por cierto por un consejero del anterior gobierno socialista

de la viceconsejera de vivienda sobre rentas de alquiler en el parque de viviendas del departamento de empleo y políticas sociales mediante la aplicación de esta instrucción

de la unidad convivencial dicha medida se aplica con carácter universal y si se constata que la renta calculada conforme a la orden de precios dos mil diez rebasa el treinta por ciento esa renta

alcanzar ese porcentaje por lo que respecta al gasto de comunidad

euros una media de sesenta y cinco euros por vivienda

un trastero y una plaza de garaje estamos hablando siempre de repercutir los gastos ordinarios generados por ascensores portales puertas de entrada a garajes suministro de electricidad a todos estos elementos la limpieza de los portales descansillos trasteros

porque los gastos extraordinarios tales como arreglos de cubiertas de las fachadas

las paga siempre el gobierno es decir todos los contribuyentes nosotros queremos poner énfasis en promover el sentido de la responsabilidad de los inquilinos

en función de que se haga un mejor o peor uso del edificio que los usuarios

conlleva un uso más racional de energía y del gasto por su parte hay otra cuestión sobre este

a una media de sesenta y cinco euros al menos de gastos comunitarios arroja una cantidad de

a cargo de la administración pública en resumidas cuentas señorías es tanto la recalificación de vivienda en venta a vivienda en régimen de alquiler en la forma propuesta por el grupo socialista

ponen en riesgo la sostenibilidad económica de visesa y alokabide

del parque público de viviendas en alquiler por eso señorías votaremos en contra de la propuesta inicial y mantendremos nuestra enmienda de totalidad eskerrik asko

sí gracias presidenta buenas tardes nosotros sí que votaremos a favor de la iniciativa original compartimos la filosofía y lo que efectivamente

ni de totalidad compartimos los dos puntos el primero lo que propone

gestionado por alokabide aquellas viviendas construidas en régimen de compra y que lleven más

sin adjudicar es decir que de las seiscientos viviendas de visesa doscientos setenta y cinco llevan más de doce meses sin adjudicar y lo que se propone es que estas pasen

estamos de acuerdo y compartimos también el segundo de los puntos algo que ya se ha debatido en este parlamento en alguna otra ocasión y de hecho algo parecido a esto o exactamente lo mismo ya se aprobó en una comisión de hecho se aprobó una enmienda

el grupo socialista por lo tanto votaremos a favor de la iniciativa original upyd propugna

el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna seguimos defendiendo como siempre lo hemos hecho que los gobiernos y en concreto el gobierno vasco destine

la vivienda pública de alquiler independientemente por cierto de que haya ciudadanos que prefieran vivienda pública en propiedad lo más justo en nuestra opinión

en alquiler evidentemente esto cuesta dinero pero las políticas públicas cuestan siempre dinero se trata en este caso también de priorizar y el gobierno debe priorizar por lo tanto en nuestra opinión el gobierno debe destinar los recursos públicos a fomentar exclusivamente vivienda pública de alquiler

mantenida por cierto en el tiempo cabe hacer un breve análisis de la vivienda que se está ejecutando en euskadi y el régimen de vivienda que demandan también los ciudadanos el número de vivienda sin adjudicar que se encontraban en la situación descrita en la iniciativa original del grupo socialista

pregunta del grupo socialista es de seiscientos por parte de visesa y novecientos nueve en promociones privadas de estas seiscientos doscientos setenta y cinco llevan

el gobierno no tiene datos hemos podido conocer que desde el gobierno vasco a fecha de treinta de agosto de dos mil catorce la oferta global de vivienda en régimen de alquiler

mientras que los solicitantes de este tipo de vivienda ascienden a

la oferta cubre únicamente el veintiséis por ciento de la demanda mientras que las vivienda en régimen de propiedad que están vacías a fecha treinta de septiembre de dos mil catorce

sociedad pública visesa y novecientos nueve de promotores privados

en la dirección contraria de lo que habitualmente se anuncia mientras que los ciudadanos demandan alquiler debido entre otras cuestiones a que no hay créditos para adquirir vivienda vpo el gobierno promueve vpo en régimen de propiedad la construcción de vpo puesta en marcha en el año dos mil catorce es de ochocientos noventa y seis viviendas

ciento treinta y cinco en derecho de superficie y ninguna en régimen de alquiler en conclusión parece razonable que el departamento de vivienda intervenga para revertir

para las que no encuentra adjudicatario o bien o quizás también

de viviendas en régimen de alquiler por otro lado es necesario señalar que entre los objetivos globales del plan director de vivienda dos mil trece dos mil dieciséis para el año dos mil catorce aparece la promoción de mil ochocientos cincuenta viviendas

mientras que para el año dos mil quince por primera vez la promoción de vivienda en alquiler iba a ser superior a la de venta

entre los que realmente creemos que el alquiler es una clara apuesta de las políticas públicas en materia de vivienda además

el impulso decidido al acceso a la vivienda en régimen de alquiler fundamentalmente destinada a favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables se ha dicho el consejero el señor aburto recientemente

entusiasta militante de upyd decía que con dinero público no deberíamos favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda compartimos esto no es que lo compartamos sino que el consejero comparte las tesis defendidas históricamente por upyd desde el año dos mil nueve defendemos esto prácticamente en solitario

hemos venido defendiendo que la vivienda pública sea exclusivamente en alquiler nos alegra esta posición teórica del gobierno pero se trata de pasar de las palabras

no parece razonable que un poder público como es el gobierno vasco tenga un parque de seiscientos viviendas vacías sin ocupar cuando existe una demanda social evidente de vivienda y de vivienda en alquiler ya digo que

dinero pero es que los servicios públicos y la vivienda pública en alquiler exigen sin ningún tipo de remedio

y hay que destinarlos en definitiva compartimos la teoría y no solamente la teoría sino también la práctica de esta iniciativa original del grupo socialista

gracias señora presidenta buenas tardes a todos

que el objeto de la proposición es un asunto que hemos debatido tanto en general

en otras ocasiones y es verdad que todos los grupos hemos dicho que es necesario una apuesta

de los poderes públicos por garantizar el derecho de toda la ciudadanía a poder acceder a una vivienda y nosotros no hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones es verdad que sobre todo

a aquellos que tienen menores recursos económicos pero que también hay que facilitárselo a aquellos que sin estar en esos umbrales que en muchas ocasiones pues

la política pública de vivienda sin embargo tampoco se encuentran en disposición para poder y menos en este momento para poder acceder

a los precios que en el mercado se establecen aquí todo el mundo o todos los grupos han hecho una defensa de la política de alquiler nosotros también lo hemos hecho en otras ocasiones pero nosotros a diferencia y nosotros no somos militantes de upyd no lo dude señor maneiro

que debe de compatibilizarse y que aunque es verdad que la política de alquiler debe ser la prioritaria en la política pública de vivienda también la vivienda o la vivienda en propiedad no debe desdeñarse aunque es también es cierto y eso lo comparto con el señor itxaso que últimamente encuentra muchas dificultades porque es evidente que las

han propiciado un retroceso en la demanda de vivienda en propiedad y un aumento de la demanda de la vivienda en alquiler

señalaba que el alquiler se revelaba como una de las opciones más viables para muchos demandantes de vivienda porque

en este momento la fórmula del alquiler es la que se está mostrando como la más adecuada para poder garantizar el acceso a la vivienda a muchos vascos la más adecuada y la más demandada sin duda es verdad que durante mucho tiempo en el país vasco existía la cultura de la propiedad y eso también lo hemos puesto de manifiesto aquí pero en este momento se están invirtiendo los datos y así el observatorio vasco de vivienda en el año dos mil trece establecía que de las ochenta y seis mil casi ochenta y siete mil solicitudes

por el alquiler convirtiéndose por tanto en el régimen de acceso más solicitado y a este dato también

a los solicitantes de vivienda en propiedad en el primer caso

veinte mil quinientos euros anuales desde el grupo

y también lo hicimos cuando se debatió el plan director de vivienda que nosotros

preponderante apostábamos por el alquiler por las políticas públicas de alquiler y también en la proposición de ley de vivienda en este momento en trámite también así

que también en materia de alquiler las promociones privadas tienen teniendo un papel fundamental frente a las promociones públicas sigue habiendo una mayor

en alquiler y además hay que decir que los alquileres en euskadi son de los más elevados y por lo tanto hay que tomar medidas que consigan alquileres más baratos y nosotros lo hemos defendido aquí lo estamos defendiendo ahora en la ponencia de vivienda y lo vamos a seguir defendiendo que apostamos claramente por medidas de acción que estimulen que ofrezcan garantías y que ofrezca mayor seguridad a los propietarios de las viviendas para que los pongan nuestra política siempre ha pasado y va a seguir pasando por incentivar y no por castigar por estimular y no por penalizar debemos ser conscientes de que la vivienda vacía

y es necesario poner en el mercado esas viviendas pero

pero también hemos sabido que según el observatorio vasco de viviendas las viviendas desocupadas gestionables es decir que no están ni en venta ni en alquiler y que podía movilizarse para responder

luego vemos por tanto que solo una mínima parte de esas viviendas son las que se han

desde las políticas públicas utilicemos medidas de fomento incentivadoras medidas positivas para captar esas viviendas y si tenemos que captar viviendas privadas para ponerlas en el mercado del alquiler cómo no vamos a hacer con las viviendas en propiedad las viviendas que nosotros tenemos las viviendas públicas aquí se ha hablado de distintas cifras

ahora seiscientos bien la cifra yo creo no es lo de menos evidentemente porque a mayor número de viviendas mayor posibilidad de ponerlas en el mercado pero creemos y en eso lo compartimos

favorablemente que estas viviendas que son viviendas públicas deben
pasar a formar parte del alquiler pero deben pasar a formar parte fundamentalmente porque isiltasuna mesedez se ha demostrado que en este momento
no están siendo adquiridas es verdad que se han utilizado distintas fórmulas la del alquiler con opción a compra la de pago aplazado pero no están saliendo en este momento no existen posibilidades

demanda en alquiler creemos que es verdad que visesa

puede tener problema pero eso al final son operaciones contables y lo que se destine

es inversión en política de vivienda invertir en política de vivienda se puede invertir de muchas formas y al final trasladar esas viviendas o comprarlas si se quiere el gobierno vasco para después destinarlas a alquiler social es invertir en política de vivienda porque invertir en política de vivienda no supone ponerla en los presupuestos de dos mil catorce que ponerlas en los presupuestos de dos mil quince no

supone ejecutar esos presupuestos el señor consejero decía que

en compra al de arrendamiento lleva su tiempo no no si tiempo debe llevar aquí tiempo lleva todo en el departamento de acción social todo lleva un tiempo pero bien no hay más que ver el tiempo que está tardando de organizar lanbide aquí tiempo

ya y creo que tener una vivienda que en este momento está en propiedad que lleva mucho tiempo sin venderse que además se han dado distintas fórmulas

el destinarla en alquiler creo que eso es invertir en política

porque como digo el papel lo aguanta todo pero un plan y una política presupuestaria de vivienda después se tiene que aplicar y cuando como digo cuando

porque tienen viviendas vacías que no utilizan me parece que no se puede ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio

yo creo que eso no es irresponsabilidad y con relación al segundo punto

aquí en otras ocasiones no sería más que aplicar a estas viviendas que van a formar parte de ese parque de viviendas que van a ser alquiladas de una determinada manera

previstas en las dos instrucciones que hemos debatido en otras ocasiones en esta cámara yo creo que es verdad que hay que

no pueda suponer un importe superior al treinta por ciento de los ingresos de la unidad convivencial nosotros queremos dejar claro porque

apostamos mayoritariamente por la política de alquiler sin que eso suponga

de vivienda pública en propiedad pero creemos que cuando las administraciones públicas en algunos casos refiriendo a entidades privadas o a entidades financieras y se les está criticando porque tienen y desde aquí lo hemos hecho

lo que no se puede hacer es criticar a otros lo que uno no hace por eso
nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea isiltasuna mesedez

en primer lugar agradecer a los grupos que van a apoyar la propuesta como no puede ser de otra forma

al partido nacionalista que se opone a la iniciativa decirle algunas cosas recordar que bajo el gobierno socialista

que corresponde la política de alquiler se incremento en un veinticinco por ciento esto es el hecho real

solo se han iniciado doscientos ocho viviendas de alquiler en este mandato a esto quiero mostrar que

obviamente esta es una realidad que para la opinión pública para aquellos que demandan acceso a la vivienda en condiciones

esto no deja de resultar paradójico si además el propio gobierno

y no solo dice que favorece la política de alquiler porque lo ha dicho en fin he empezado citando las palabras del señor consejero que son lapidarias pero es que

y es que en la comunicación que acompañaba al plan director de vivienda decía taxativamente esto lo dice el gobierno no lo dice el señor itxaso lo dice el gobierno

la posibilidad de que el exceso de vivienda existente en régimen de compra se destine a esta opción de acceso a la vivienda

el propio gobierno por lo tanto esto no es sacar

es que es el gobierno en su plan director en la comunicación que le acompaña quien contempla esta posibilidad

claro las razones presupuestarias siempre se esgrimen como razones de estado y este parlamento entonces qué pinta cada vez que adopta un acuerdo

en ese plan director y de paso vuelvo a recordar lo que le decía en la primera intervención

la primera de las resoluciones dice el parlamento vasco insta al gobierno a realizar una reflexión que el acceso a cualquiera de ellos no suponga

y gastos de comunidad fijos incluidos que todos ellos incluyan la revisión anual

la adaptación de la renta de alquiler se haga en un plazo breve y se aplique desde el momento del cambio de situación ese es uno de los acuerdos de los que hemos hablado antes también nos hemos referido al de abril en el que efectivamente se toma como base una de las enmiendas de upyd y este parlamento se ha pronunciado esos acuerdos

con la iniciativa que hoy traemos aquí por lo tanto no nos hemos inventado una situación forzada o una interpretación

en esa comunicación del plan director en todas las manifestaciones que ha hecho el gobierno desde el comienzo de la legislatura en favor del alquiler como política de vivienda prioritaria

que hablan de esto mismo y estamos trayendo a colación un mero recorte de prensa en el que pone en evidencia la gran paradoja está habiendo una disminución de los demandantes en compra y hay un aumento

hay una serie de viviendas que no se venden desde hace ya un tiempo razonable y entendemos que la mejor manera de hacer realidad todas estas invocaciones es dándoles esta forma dándoles esa forma de decir bueno no ha podido ser

fórmulas y el informe del observatorio vasco de vivienda también lo plantea y no han dado resultado

todo eso que apelamos nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

el gobierno en las numerosas preguntas que ha hecho y sabe perfectamente que lo publicado en un medio de comunicación escrito este fin de semana los datos son perfectamente incorrectos porque mezcla conceptos básicos que inducen a la confusión confunde viviendas calificadas

exhibiendo datos de periódicos porque si hacemos política en base a los recortes de periódicos vamos mal

señora beitialarrangoitia respecto al cambio de paradigma las enmiendas y los trabajos en ponencia

repasar mis intervenciones desde el momento inicial en que se tramitó en este parlamento

no respondía a las necesidades políticas del futuro de la vivienda en euskadi por tanto no nos responsabilice a nosotros o al menos yo no me doy por aludido cuando hace esas referencias

y la recuperación de los recursos públicos empleados en estas actuaciones

creo que todos coincidimos al menos teóricamente pero que en las decisiones cotidianas como esta que nos proponen se olvida con demasiada frecuencia se olvidan de decir que el impacto económico de su propuesta asciende a más de treinta millónes y que supone consolidar

a añadir a los más de cien que se dedican anualmente a esta materia vamos a ver son especialistas señor itxaso en dejar entuertos para que resuelvan los que vienen después me resulta chocante

antes de ayer como si dijéramos y solicitan al actual gobierno que realice algo

capaces o no han querido hacerlo pero hay que decirlo claro este gobierno ha realizado más ha tomado más decisiones en favor de los inquilinos del parque público de viviendas en alquiler en los escasos dos años de gobierno

de la viceconsejería de vivienda sobre el tope máximo del treinta por ciento de los alquileres

sirve de poco destinar al alquiler las quinientos viviendas que se había previsto fueran vendidas en propiedad

pasamos de posibles compradores a futuros inquilinos pero siempre nos estamos moviendo dentro de un colectivo que reúne las condiciones para acceder a una vivienda de protección pública

lo reducimos en el número equivalente a esas viviendas porque nos seguimos moviendo en el marco de una legislación reformada seguimos parcheando una legislación que seguramente no da más de sí

son los efectos colaterales de ese tipo de decisiones decisiones como las propuestas por ustedes suponen seguramente la quiebra el cierre de visesa y esto que supone pues supone entre otras cosas

la consiguiente eliminación de entorno a setenta y cinco puestos de trabajo en el sector público algunos que les preocupa tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector público

las palabras son más débiles que los hechos ustedes dicen que para el cálculo del esfuerzo económico que tiene que realizar el inquilino

sin embargo son incapaces de ponerlo en práctica en los municipios que gobiernan

o en el de donostia o laudio respecto a bildu

la pelea que se trae sobre el cumplimiento de esta determinación hay que predicar con el ejemplo en la página web del ayuntamiento de donostia donostiako etxegintza sobre el alquiler de sus propias viviendas de protección oficial

del inmueble en función de la cuota de participación que se le señala en el contrato

es pura incoherencia política es populismo en el sentido negativo de la expresión adobado en este caso con una cierta dosis de cinismo político eskerrik asko

muy brevemente porque es curioso como las cosas cambian dependiendo de la posición que cada uno adopte en su momento siendo gobierno

o siendo oposición porque muchas de las cuestiones

aquí se alude a la responsabilidad es un momento no sé si por irresponsabilidad o por estar en la oposición eran exigidas por parte del partido

yo no sé si otros grupos yo he defendido aquí y estoy defendiendo en ponencia y quienes están conmigo en la ponencia lo saben que prioritariamente tiene que ser de alquiler pero que no hay que abandonar las políticas públicas de viviendas en propiedad y lo estoy defendiendo

una responsabilidad que realmente es verdad que visesa estuviera en este momento pudiera

esos inmuebles que es verdad que en su momento fueron hechos para ser vendidos y que con la obtención de esos ingresos públicos se pudiera hacer política pública en este caso y parece que ahora sí solamente de vivienda pública en alquiler pero es que eso no está sucediendo es que lo que tenemos en este momento es un parque de viviendas vacío porque no se vende

y mientras tanto estamos utilizando recursos públicos para dar las prestaciones complementarias de vivienda que hay que darlas

sin embargo no estamos utilizando otros recursos como pueden ser las viviendas que en este momento disponemos

y las de las seiscientos viviendas lo ha duda usted señor aldaiturriaga

de que en este momento hay mucha más demanda en alquiler que en propiedad

pero sería un paso pero me hace gracia que cuando las posturas

y usted en su primera intervención ha hablado de que las deudas hay que pagarlas que los compromisos hay que cumplirlos pero el representante del partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados le exige al gobierno del partido popular que se olvide del déficit que hombre eso haber pero aquí no aquí las deudas hay que pagarlas los compromisos hay que cumplirlos y si se dice otra cosa es voluntarismo político lo que le digo

la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y yo mire yo estoy solo de acuerdo en usted

y me va a permitir señor itxaso que utilice una expresión que utilizan los jóvenes porque yo no me califico ya de joven que utilizan los jóvenes

pues yo le digo lo mismo que rule esta medida que hable usted con ayuntamientos suyos y que hablen con la junta de andalucía que tienen un montón de pisos vacíos

hay centros educativos que tienen entre su alumnado un alto porcentaje de alumnos y alumnas inmigrantes minorías étnicas y en general también grupos sociales muy desfavorecidos la prueba de evaluación internacional del alumnado de quince años

nos trasladó una serie de datos por primera vez se superaba la media de la

los resultados del alumnado inmigrante han sido
muy bajos en esta ocasión haber mesedez isiltasuna más alejados de la media

de nuestro entorno el consejo escolar de euskadi en sus informes sobre la situación de la enseñanza en la comunidad autónoma vasca

a los centros de un perfil socioeconómico más bajo sea cual sea su titularidad y esto es muy importante sea cual sea su titularidad

centros concertados ha reiterado nuevamente el consejo escolar que estos centros necesitan recursos suficientes

mayores niveles de éxito escolar en aras a garantizar una mayor equidad en la educación de los jóvenes vascos en este sentido ha manifestado que tanto los centros con bajo isec

del alumnado como los centros que tienen ya de por sí un número de alumnos de inmigrantes un número alto

mayores recursos como decía independientemente de la red a la que

lo mismo en todas las redes y es bueno que nos preguntemos cómo están respondiendo los centros públicos y concertados a la atención a la inmigración porque el debate en los últimos años parecía circunscrito a que

recogen y atienden en mayor medida casi en exclusividad a las familias con inmigrantes son los centros públicos

carga soporta en este caso estamos hablando de un índice medio de atención al inmigrante del diez por ciento alrededor del diez por ciento

es desigual los centros de iniciativa social pertenecientes a

tienen índices de inmigración de media alrededor del siete por ciento en cambio la red de ikastolas partaide solo atiende

muy poco superior al dos por ciento sería la red más insolidaria mirásemos desde ese punto de vista las ikastolas privadas las ikastolas de partaide no abren sus puertas a la inmigración solo en un dos por ciento ninguno de ellos ninguno de los centros ninguna de las ikastolas ha concentrado en ningún centro niveles

superiores al siete por ciento de inmigrantes y además cuando pensamos y a qué inmigrantes atienden las ikastolas privadas uy qué curioso son

principalmente de la unión europea del norte de américa etcétera no de países

necesidades en cambio cuando nos referimos a la enseñanza concertada en global sí que vemos que hay centros

hay muchos centros concertados que lo soportan y yo creo que hoy es importante que analicemos los datos y que nos fijemos y por eso hemos querido traer el debate que es un debate distinto

no queremos volver a traer aquí la repetición de debates que tienen que ver con la inclusión con la inclusividad o con la atención a la diversidad queremos traer una vez más la preocupación sobre lo que está ocurriendo en determinados centros en un número muy reducido de centros de nuestra comunidad centros concertados pertenecientes a centros diocesanos o pertenecientes a kristau eskola que soportan tasas de inmigración atención

y me quiero referir a ellos porque son diez señorías diez centros concertados superan la media de atención a la inmigración de la red pública

en vitoria el hogar san josé con un cuarenta y dos casi cuarenta y tres por ciento de alumnado inmigrante en barakaldo la milagrosa

en bilbao ángeles custodios con un cuarenta y dos por ciento de alumnado inmigrante en bilbao también la fundación peñascal con un sesenta y dos por ciento de alumnado inmigrante concertado otro centro en bilbao ibaigane ya cerró también soportaba cifras del veinticinco por ciento este ya cerró también en bilbao presentación de maría el recuerdo hijas de la cruz

en bilbao también san pedro apóstol cuarenta y tres por ciento de alumnado inmigrante en bilbao también santa maría de artagan veinticuatro por ciento de alumnado inmigrante

santa maría del socorro cuarenta y ocho por ciento de alumnado inmigrante donostia presentación de maría

cincuenta y cinco por ciento de alumnado inmigrante san josé también en donostia

sesenta y siete por ciento de alumnado inmigrante la inmaculada en hernani supera ya el treinta por ciento de alumnado inmigrante

que están en este momento en riesgo serio de cierre centros que no pueden soportar el esfuerzo que vienen haciendo desde hace ya muchos años para atender especialmente a aquellos niños y niñas que pertenecen a familias especialmente

económicos centros que reciben exactamente el mismo módulo de concierto que los centros concertados que atienden a los niños y niñas de familias de clases medias acomodadas etcétera en bizkaia en gipuzkoa y en álava diez centros que necesitan en nuestra opinión específica un programa de atención y de recursos específicos exactamente igual que esta mañana un grupo político nos hablaba oiga que es que hay algunos centros hay algunos comercios que están abocados al cierre si no se les ayuda y hay puestos de trabajo en riesgo también aquí hay centros

les abocaremos al cierre diez centros concertados en nuestra comunidad que tienen tasas de atención al alumnado inmigrante superiores al treinta por ciento como he dicho

por ciento centros que llevan muchos años manteniendo un compromiso firme y decidido con los valores de una dedicación integradora inclusiva atendiendo a la diversidad ayudando a las familias con mayores problemas

y atenazadas por la crisis económica por la falta de trabajo y la falta de oportunidades centros que con un especial interés han acogido alumnos

que han abierto sus puertas y que en muchos casos también han sufrido la fuga de otros alumnos porque

en el momento que esos centros abren sus puertas a la inmigración deciden emprender un compromiso firme

también sufren la fuga de otros alumnos exactamente por ese mismo hecho estos centros que asumen ese esfuerzo

habíamos reclamado a la red concertada y a muchos centros concertados oiga ustedes también tienen que colaborar

esto no puede ser algo que solo se resuelva no es algo a lo que solo se le dé respuesta

y cuando los centros concertados se comprometen no están recibiendo programas de apoyo complementario ayudas sí pero sí las que vienen

con una propuesta que viene a decir que se sigue haciendo lo que ya se viene haciendo oiga si se sigue haciendo solo lo que ya se viene haciendo estos diez centros que les he mencionado cerrarán porque llevan años sufriendo pérdidas que están siendo sufragadas por sus propias congregaciones religiosas y usted lo sabe y

que no pueden sufragar el coste de los alumnos mire es verdad

abordar un problema específico con soluciones específicas estamos hablando de que un trabajo discreto que llevan realizando determinados centros

reconocer su trabajo y reconocer su compromiso pero es que no solo nos podemos quedar en el reconocimiento de su trabajo y de su compromiso no basta ya con decir que el gobierno debe seguir apostando por la diversidad y por los refuerzos

no solventamos la viabilidad y la continuidad de sus proyectos educativos estos centros concertados no tienen acceso

de libros de texto estos centros educativos por ser concertados no tienen acceso a la gratuidad de los libros de texto no tienen acceso no tienen un tratamiento específico porque a la hora de asumir

no se les ha planteado por ejemplo una rebaja del ratio alumno aula para mantener los conciertos nosotros creemos que merecen medidas específicas señorías lo que estamos planteando es que esos centros en atención a su peculiaridad a su situación peculiar y a su esfuerzo especial reciban

igual que un centro público la oportunidad de acogerse al plan de prestamo y de gratuidad de libros de texto que

una rebaja en la ratio alumnos aula para obtener o poner mantener los conciertos educativos porque están perdiendo conciertos también

que se puedan acoger

a nuevos planes de ayudas económicas no solo que también

los programas que ya tiene el gobierno los tenemos aquí numerados efectivamente nos los ha contado el gobierno en relación

con las preguntas parlamentarias pero esto no puede ser una cuestión que solo dé rentabilidad no no es que tenemos que hablar de la rentabilidad social

no basta con aportar profesores de refuerzo no basta con cuestionar los planes metodológicos no basta con decirles oiga pongan ustedes en marcha los planes de interculturalidad

son un ejemplo de proyectos educativos interculturales inclusivos

un ejemplo de compromiso en ese aspecto esos son los proyectos

pero además nosotros queremos trasladar una propuesta nueva exactamente que hubo un momento y durante muchos años se plantearon conciertos al cien por ciento módulos al cien por ciento

en la euskaldunización oiga a los centros ustedes aquí

nosotros lo que estamos planteamos es conciertos complementarios

de inmigración superiores al treinta por ciento para los centros concertados que asumen tasas de alumnado inmigrante superior al treinta por ciento conciertos complementarios

que les garanticen un veinte por ciento más del módulo eso supone muy poco dinero estamos hablando de no muchos centros pero supone
garantizar la continuidad de esos proyectos educativos isiltasuna

refuerzo a los programas de diversidad refuerzo docente

pero sobre todo refuerzo económico para garantizar la vida y los proyectos educativos de esos centros necesitamos reconocer exactamente y apoyar

un mayor compromiso social y he puesto diez ejemplos seguramente con

seguramente igual puede salir algunos más pero creo que estos centros son un ejemplo de compromiso social

tendremos un goteo de cierre de centros el año pasado fue ibaigane en bilbao hay diez centros en riesgo independientemente de que se pueda cuestionar o no la gestión hay diez centros que exactamente con una gestión

están teniendo muchas dificultades para salir adelante que en este caso no basta con la transacción que nos han repartido firmada por eh bildu y el pnv no basta con eso necesitamos respuestas respuestas

usted me dice empezando por el final que no está de acuerdo con la transacción que ha firmado partido nacionalista vasco con eh bildu no es suficiente pero si es usted lo que pone aquí

señor oyarzabal entonces viene usted aquí

si hacer un alegato en contra de las ikastolas si hacer un alegato a favor de diez centros concertados

de qué estamos hablando centre el debate señor oyarzabal vamos a centrarnos de qué estamos hablando

es decir en la comunidad autónoma tomando el sistema educativo en su generalidad el cincuenta y cinco sesenta por ciento de los centros educativos

alumnado recién llegado es menos del cinco por ciento y en un diez por ciento se concentran a partir del veinte o treinta por ciento esas son los datos que se cifra en la comunidad autónoma de eso se trata de qué hacemos

pero es que usted nos viene aquí y nos empieza a decir eso que haber qué es lo que vamos a hacer mire usted nosotros planteamos tres cuestiones tres cuestiones a los que hacer que van en la línea de lo que se planteaba

nosotros este es el debate que se dio usted mismo trajo este mismo debate el

de este mismo año en esta misma cámara usted además creo que firmó lo que hoy aquí nosotros hemos consensuado entre el partido nacionalista vasco y eh bildu entonces pues no sé de qué hablar

que yo quería dar entonces hay tres cuestiones que nosotros planteamos señor oyarzabal

cien mil euroko jaitsiera egon da ikastetxe kontzertatuetan señor oyarzabal que no lo ha dicho

en los presupuestos del dos mil quince con respecto al dos mil catorce

por lo tanto es importante porque nosotros así se lo vamos a exigir al pnv que firme

van a invertirse más recursos en lo que respecta a la atención

de la interculturalidad y a la atención del alumno alumna inmigrante en los centros educativos públicos y concertados ese primer punto

una cuestión que usted ha comentado pero se le ha pasado al final no sé qué

ha ligado diez centros que con una tasa de inmigración oscilan entre un treinta subían del sesenta por ciento que hay centros públicos que tienen el ochenta y más del ochenta por ciento señor oyarzabal no se olvide usted lo que ha hecho ha sido decir que en esos centros el problema va a ser

cuáles son las características y en función de eso dotarles de recursos y

hacer un plan que encamine a la no ghettización de algunos centros eta hirugarren kuestioa da mire usted askotan

si hace falta que bajen las ratios si hace falta que los libros de texto sean

conciertos complementarios es que igual hay que pensar también otra serie de cuestiones

nosotros lo que queremos es que traiga el departamento aquí cuál es la propuesta que tiene y que va a llevar adelante

que es por otra parte lo que se acordó en junio uno y dos

leídas las dos iniciativas digamos tanto la propuesta original como la enmienda de transacción a la que se ha llegado

que las dos son razonables con lo cual pues votaré a favor

gaiari por tanto no hablamos de nada extraño se trata de un problema que preocupa al departamento de educación desde hace mucho tiempo

y como también afirmó la señora celaá existían al respecto varios planes elaborados por el gobierno anterior que se pondrían en marcha en esta legislatura se trataba del plan de atención educativa al alumnado inmigrante

años dos mil doce dos mil quince y el plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva dos mil doce

y también otro tipo de proyectos con origen en esta nueva legislatura como puede ser hamaika esku todos estos planes donde se recogen medidas concretas ante una problemática real pero que está concentrada en centros muy específicos

tiene nada que ver en este aspecto horrela bada eh bilduko

está dotado de recursos en los presupuestos de la comunidad por cierto en el año dos mil doce estaba dotado de dos millónes doscientos setenta y cinco mil euros en el dos mil catorce

y para el dos mil quince lleva un millón quinientos mil euros claro no todo son recursos económicos

y es verdad que estén donde estén las necesidades han de ser atendidas por tanto nosotros estábamos de acuerdo con la posición que tenía el proponente el señor oyarzabal también estamos de acuerdo

en una retórica en una retórica bastante importante bastante importante porque claro estando de acuerdo con lo que decía el señor oyarzabal en su propuesta de saque ciertamente luego aquí en la tribuna

pues también es convincente es decir sabemos

centros concertados que requieren atención especifica y eso tiene que ser atendido por el gobierno en debida forma pero es que tiene que ser atendido es decir viene siendo atendido lo que no se es si ha sido atendido convenientemente en el dos mil trece

y va a ser atendido en dos mil quince porque efectivamente aquí hay una reducción de recursos

y nosotros lo demandemos pero también estamos de acuerdo con la posición transada por qué pues porque señorías es la red pública la que escolariza

es la red pública en una cuantía superior al sesenta por ciento pero además no es lo mismo no es lo mismo incluir

que la inclusión es un concepto muy superior a la integración porque en la integración el que viene tiene que de alguna manera incorporarse y adaptarse a lo que existe mientras que en la inclusión

llega a acoger primero esa multiculturalidad resultara en una interculturalidad lo que quiero decir es que

ciertamente la red pública ha llegado a tener

diferentes porque claro no es lo mismo integrar incluir a una persona que viene de colombia

de rumania o de china es decir la lengua extranjera introduce un factor de complejidad mayor

y la inmigración forma parte de la diversidad señorías nos pongamos como nos pongamos igual que el resto de necesidades educativas especiales

por tanto he de decir que la escuela es el único microcosmos social conscientemente organizado

donde debemos operar precisamente en la escuela en la escuela para llegar a la

a la inclusión que obviamente tiene un camino de integración y para ello se requieren recursos cómo no recursos materiales se requieren recursos materiales se requieren refuerzos lingüísticos pero sobre todo se requiere un proyecto educativo de centro que tiene que estar adaptado a esa diversidad

unas direcciones consolidadas y estables un equipo profesional un equipo profesional desde luego con sensibilidad y con conciencia moral para saber

tiene que destacar precisamente a las personas diferentes y en colaboración con las familias conseguir los mejores resultados ciertamente señorías ustedes nos han metido en un poco en un debate retórico de tal manera

nos parece todo bien nos parece todo bien pero sobre todo nos parece bien que esos diez centros que hoy ha subrayado el señor oyarzabal sean atendidos pero que también sean atendidos todos aquellos centros todos aquellos centros que teniendo un bajo isec

u otra diversidad requieran desde luego de la atención especifica del departamento de educación pero a este respecto hay quien demanda un plan pero claro no vamos a volver

porque existe ese plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva presentado el diecinueve de abril de dos mil doce y que tiene factor temporal dos mil doce dos mil dieciséis y que tienen ustedes aquí del gobierno anterior y que recoge todas estas cosas de las que estamos hablando por lo tanto

hace falta atenderlo adecuadamente y esos diez centros

tienen que ser atendidos adecuadamente conforme a sus necesidades por tanto señorías nosotros

del proponente y vamos a votar a favor también de la posición transada si bien he de decirles que desde luego mi sorpresa es grande cuando

instan a que la viceconsejería de educación presente en la comisión de educación las medidas

siempre es el jefe del departamento o la jefa del departamento pero no la viceconsejería de educación que no sabemos

autoridad va a hablar a la comisión de educación para aportar o dar respuesta a las peticiones del punto anterior no obstante nos parece que esta es una cuestión

que ustedes deben corregir porque esto así nunca ha sido y que de todas maneras no vamos a estropear la esencia del contenido

yo me alegro mucho de que todos coincidan en la propuesta del partido popular es verdad que coincidíamos tanto

mi propuesta que inicialmente les parecía muy razonable a todos

firman una transacción con el pnv para seguir haciendo lo que ya se viene haciendo o sea que es que los que tienen problemas sigan teniendo los mismos problemas

en estos últimos tres años en relación a la atención a la inmigración pero es que

que tenían muchos problemas las más desfavorecidas todavía han tenido sus problemas más agravados los centros que asumían las mayores tasas de inmigración estos diez a los que me refiero además de tener tasas del treinta del cuarenta del cincuenta y del sesenta por ciento

son alumnos que provienen de familias

con problemas y no pueden tener el mismo tratamiento por ser concertados

que asumen un compromiso social desde hace ya muchos años reciben el mismo módulo de concierto que las ikastolas pero las ikastolas no asumen el mismo compromiso social además sabe

como los conciertos educativos que habría que revisar aquí está el lehendakari y vamos a aprovechar para reclamar una revisión de los conciertos educativos porque

no logran suplir lo que significa el coste por alumno en la red concertada hay que revisar los conciertos al alza pero claro las ikastolas privadas determinados

pueden colocar una cuota extraordinaria

las familias del centro pueden pagar los comedores bueno pueden pagar actividades extraescolares

necesitarían tener un tratamiento como el de la escuela pública como el de cualquier centro público están asumiendo todas sus responsabilidades y todos sus compromisos

las familias que acuden a estos centros no pueden afrontar las cuotas del centro no pagan las cuotas del centro no

las becas son temporales las becas de comedor y no pagan el comedor pero siguen yendo al comedor escolar

tienen dificultades para adquirir los libros de texto porque sus familias no pueden comprar libros de texto pero como son centros concertados no tienen acceso a la gratuidad

esas familias tienen problemas añadidos que necesitan respuestas específicas son centros de iniciativa social y desde luego creemos que está en juego su supervivencia un centro que cada año registra unas pérdidas que como hay datos ya

qué le décimos que le ponemos un profesor más de refuerzo pues eso está muy bien y por supuesto que hay que seguir manteniendo los programas

tenemos que reforzar los módulos de concierto por eso estamos planteando propuestas alternativas los centros que están atendiendo como si fuesen un centro público la diversidad las altas cotas de inmigración a los alumnos con datos más conflictivos o con peor dato de isec a esos centros creo que hay que abordar señor

arrizabalaga y el señor agirrezabala esto es un lío pero bueno ustedes se ponen de acuerdo para lo que quieren

o sea que mis propuestas están bien y a usted le parece muy bien pero que igual hay otras oportunas claro pues seguramente habrá otras y para eso está la administración para buscar

distintas a las que se vienen aplicando usted necesita ahora que en el dos mil quince un nuevo plan le acaban de decir un nuevo plan en el dos mil quince

cuánto tiempo llevamos oyendo aquí hablar de la atención específica

cuánto tiempo llevamos hablando de combatir la ratización en los centros hace quince años usted tuvo responsabilidades de gobierno

tuvo responsabilidades de gobierno ustedes el pnv también

públicos y concertados pero lo que estamos hablando es que por supuesto

está comprometida con su sostenimiento pero en cambio hay unos cuantos centros concertados que están asumiendo las mismas responsabilidades los mismos compromisos que un centro público pero no reciben la misma atención

abordar este problema que es específico que desde luego es un problema

desde luego haciendo un esfuerzo enorme en los últimos años por mantener ese compromiso y yo creo que es de recibo
que ante ese problema específico se les dé una solución también específica nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna eh bilduren ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

da celaák andreak esaten zuena da que no entendía por qué a la viceconsejera de esto

se firmó el veintisiete y es que lo acordamos prácticamente todos de todas formas eso no es lo importante lo importante es

y yo repito nosotros lo que queremos es uno más recursos dos analizar todos esos centros que han salido

atención aparte de estos diez como decía la señora celaá que estoy de acuerdo es decir aparte de estos diez cuáles son identificarlos

y tercera cuestión ver qué medidas hay que tomar porque en el tema de la concertación usted sabe en este momento usted ha abierto aquí ha abierto un debate

un debate que es muy amplio el tema de la concertación porque usted sabe perfectamente que en los centros públicos también cómo se elaboran las plantillas

gelas hay y en función de eso hay ratios de profesorado establecido

sí hay una concertación por aula y después la necesidad de respuestas alumnado inmigrante llámese prl

para eso hay una serie de subvenciones que es lo que le decía yo anteriormente que es esto presupuestos

para este año dos mil quince o los ochocientos mil que están contemplados para la secundaria es eso

otra cuestión es que lo que tenemos que ver si es suficiente o no y yo le decía antes a la señora arrizabalaga que no es tan difícil señora arrizabalaga no es tan difícil

si eso es realmente si es suficiente o no nosotros entendemos que no porque hay una bajada

lo que tenemos que hablar por lo tanto nik uste dut eta jada edukira joanaz

mahaiburu andrea señora celaá señor maneiro no se encuentra en este momento a nosotros nos parece muy bien que todo les parezca

que el señor oyarzabal nos ha hecho trampa y es que lleva un año y medio presentado

de dónde viene ese tercer punto que está recogida en la transaccional este debate se pospuso el día veinticuatro de septiembre y era un compromiso adquirido este tercer punto por lo que también lo hemos recogido en el pleno de hoy

han comparecido anteriormente viceconsejeros en comisión por tanto entiendo que no

importancia y entonces la cuestión es que nos sentimos un poco engañados por usted señor oyarzabal porque lo que estamos haciendo hoy aquí

asegurar los recursos humanos y materiales a los centros con un alto porcentaje de alumnado inmigrante

usted pedía sea cual sea la titularidad y luego ya lo ha ido obviando pero usted ahora se desmarca no firmando la transacción si lo que usted quería era hablarnos de centros concertados de medidas concretas para esos diez centros que usted ha nombrado aquí entonces presente la proposición

espero y agradezco que apoye nuestra transacción

para decirles que nos extraña tanto ese tercer punto porque miren a nosotros la cámara no nos lo permitió

explicitar una cuestión específica de la viceconsejería de educación

el cambio de fórmula nos extraña profundamente y desde luego decirles que mantenemos y sostenemos este plan estratégico de atención a la diversidad que tiene un marco temporal dos mil doce dos mil dieciséis

en el que tomaron parte tanto los equipos directivos de las dos redes educativas

como las federaciones y asociaciones de familias que representaban a diferentes colectivos como las universidades vascas como el consejo escolar de euskadi

y como otras organizaciones que trabajan con minorías tales como caritas iniciativa gitana

nos parece que tiene la suficiente representatividad que tiene la suficiente fuerza que sigue las directrices de la unesco que lo que hace es poner precisamente subrayar la importancia de atención a la diversidad

un buen documento de trabajo como para que este gobierno continúe con él por un principio estricto mínimo de coherencia